la verdad es que algo de esto le ha dicho el señor barrio y es que ustedes como bien saben o veo que van no se puede presentar en el mismo periodo de sesiones el mismo asunto más de dos veces y claro yo leía la interpelación que le realizó usted la semana pasada al consejero y mi sorpresa era que del planteamiento inicial al contenido de la misma

que teniendo relación en el sustantivo creo que en lo demás no tiene nada que ver el plan de empleo del origen de la iniciativa

sobradamente en esta cámara estas cuestiones están yo creo que bastante claramente fijadas por todos los grupos y desde luego también hay que marcar un campo de juego yo creo para no hacernos trampas en el solitario si venimos a contar nuestro libro exclusivamente sin ningún ánimo de aportar pues está muy bien pero yo creo que no nos podemos engañar en dos cuestiones por lo menos una cuestión que nos viene marcada porque el capítulo primero no puede crecer en este año

cuestión también para cualquier persona que conozca las tareas de gobierno y creo que todos los que estamos en esta cámara así es es que un gobierno tiene pluralidad de servicios públicos pluralidad de inversiones y por lo tanto

moverse en ese ámbito y con este campo de juego es con el que tenemos que gestionar los trabajadores públicos y el empleo público

yo sí hago una petición y en la enmienda que presentamos es que a la mesa general se retome el diálogo con los sindicatos que ahora mismo está roto no solo porque algunos sindicatos se han levantado de la mesa sino que yo creo que tampoco fluye el diálogo entre los dirigentes del gobierno y los

y ahí sí que es necesaria retomar una relación de confianza que no tiene porqué plasmarse en acuerdos necesariamente porque son tiempos difíciles para llegar a acuerdos

entre los representantes sindicales y los representantes del gobierno es fundamental para el buen funcionamiento de la administración y para engrasar acuerdos

y un ejemplo de esa ruptura de la confianza o de la falta de confianza que existe entre los sindicatos y el gobierno yo lo pondría en un ejemplo muy concreto que es la instrucción

anualmente o viene dando anualmente para contener los gastos de personal donde se dan unas pautas de cómo se hacen las acumulaciones de tareas las sustituciones etcétera bien esta instrucción ha sido solicitada por parte de los sindicatos al equipo de función pública y estos lo han denegado bueno pues a mí me sorprende es un ejemplo nimio sí pero

para que las relaciones fluyan adecuadamente decía la señora arrondo que el señor

y yo que hemos presentado un orden del día hombre usted además de presentar un orden del día usted ha presentado la plataforma del gobierno

esas cuestiones competen al gobierno al parlamento le compete orientar cada uno desde su iniciativa política las políticas del gobierno con mayor o menor éxito y es lo que hemos tratado de hacer nosotros hemos puesto jornada anual porque creemos que se puede aplicar

y además en otras administraciones vascas se está haciendo también con una aplicación desigual de la jornada anual y lo ponemos como un punto

en su moción no era mi intención hacer un orden del día pero si usted lo ha interpretado así era simplemente plantear aquellas cuestiones que me parecen interesantes

una de ellas porque además nosotros consideramos y lo hemos venido diciendo que

asumiendo la que marca el gobierno de españa es especialmente dañina en dos sectores en concreto pero uno específicamente que serían osakidetza y ertzaintza y esto

esté sufriendo especialmente los efectos de esta jornada creemos que puede ponderarse paliarse

la implantación de esta jornada anual con una reducción de los días a los que tenían derecho los trabajadores de osakidetza por su antigüedad en el cuerpo y por lo tanto al final son los más perjudicados los más mayores y las tareas que realizan algunos

requiere esfuerzo físico y sufren mucho planteábamos también

el gobierno ha decidido cuál es el régimen de sustituciones evidentemente en sanidad el régimen debería de ser mucho más flexible para que esta especial penosidad que se tiene en osakidetza no se sufra y por lo tanto

al régimen anterior también planteamos medidas de conciliación porque creo que hay que avanzar en las medidas de conciliación yo creo que hay un debate

y las medidas de conciliación ponemos también el impulso al teletrabajo porque nos consta que está en marcha pero no nos consta que se haya extendido

no me consta que todos los departamentos con todas sus potencialidades hayan extendido o asumido el teletrabajo y esa sería también otra de las cuestiones que nos parece interesante

nosotros consideramos que es necesario seguir reduciendo las tasas de interinidad que tiene la administración vasca que son muy elevadas comparadas con otras comunidades autónomas

crear empleo y crear empleo estable creemos además que a pesar de las limitaciones que nos vienen marcadas por la legislación del estado que permiten no obstante que en servicios esenciales como educación sanidad policía se hagan las ofertas públicas de empleo que sean necesarias para nosotros nos parece muy escasa la oferta pública de empleo que se ha hecho en ertzaintza nos parece que en educación debieran de sacarse todavía

en sanidad lo mismo y en administración general yo soy de las convencidas que creo que podemos avanzar más de aquello que nos marca la tasa de reposición y además me preocupa el envejecimiento natural que tiene una plantilla que entró toda a la vez con una edad muy parecida y que vamos a perder

si no planteamos si no diseñamos esas ofertas públicas de empleo y eso yo creo que tiene que ser negociado

de lakua luego también incluyo el tema del absentismo porque a mí me parece que es un tema que es importante

no se ejerce la función pública con especial penosidad y sin embargo

que en sectores de la actividad privada donde los trabajadores tienen una especial penosidad a la hora de realizar sus trabajos por lo tanto ese es un reto

del absentismo y yo creo que también es muy importante pensar porque nunca se suele dar la comunicación de la administración los que dirigen la administración en cada momento con los trabajadores comunicarles cuáles son los objetivos que tienen marcados para esa legislatura para el año

faltan herramientas y que eso también puede ser una herramienta que

además de algunas otras que tengan carácter disuasorio y por supuesto yo creo que la eterna reivindicación sindical pero también

en el gobierno socialista nos preocupó mucho fue el tema de las externalizaciones

creemos que la capacitación de los empleados públicos es suficiente

ahí habría que continuar haciendo una importante inversión en formación de trabajadores públicos para que estén a la altura para que puedan dar al gobierno todo lo que el gobierno demanda para dar

en resumen las cuestiones que siguiendo el esquema planteado por usted hemos puesto los socialistas vascos encima de la mesa no con afán de hacer el orden del día sí con afán de decir al gobierno cuáles son las preocupaciones que tenemos y desde luego y muchísimo menos tal como lo plantea usted ocupar el lugar del gobierno
a la hora de plantear la plataforma a los trabajadores públicos nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia anderea euzko abertzaleak taldearen

son las que hemos puesto encima de la mesa en el día de hoy se pueden hacer más cosas sí por supuesto

o algunas y esas son algunas de las propuestas que nosotros hemos puesto encima de la mesa por lo tanto no hablemos en general porque nosotros no estamos cerrados

a hablar de otras propuestas posibles que generen empleo porque sí estamos hablando mal que les pese a unos y a otros estamos hablando de empleo

el que más directamente nos corresponde ayudar a generar y señor barrio no nos hemos equivocado en la moción ni estamos

en estos temas recortes los hay como he dicho tanto de madrid como de gasteiz y también en iruña

y más allá de los calificativos que ha utilizado por activa y por pasiva al principio al medio y al final que sirven para lo que sirven y nada más y al que no voy a entrar repetirle

les gustaría que este parlamento aprobase estas medidas como propuesta para que el gobierno lo llevase a la mesa general para su debate y lo digo con total convencimiento como tienen también cada uno de ustedes

para hacerles llegar todas estas propuestas por lo tanto vuelvo a decir han pasado por esta casa han hablado con los grupos parlamentarios

acuerdos nos gustaría llegar a acuerdos para acabar con la pérdida de puestos de trabajo que se está dando en la administración pública y empezar a generar empleo

que además ha empezado mencionando que estaba de acuerdo en parte con el partido popular lo que le compete a este parlamento o no me parece que es un poco

hablar de ello este parlamento aprobó por ejemplo las treinta y cinco horas le compete o no le compete le compete decirle al gobierno que este parlamento desearía

a una serie de propuestas concretas por qué no le compete

a este parlamento le competerá aquello que decida que le compete porque lo demás para qué estamos aquí yo por lo menos tengo bastante claro que me gustaría trabajar para que en la medida de lo posible las propuestas fuesen lo más concretas posibles de cara al gobierno

son positivas pero no generan empleo lo que hacen es egonkortzen dute dagoen enplegua eta eajri eta modu laburrean

señora presidenta desde el escaño de manera muy breve para decir que no podemos votar la moción planteada por eh bildu porque no solo es irreal y demagógica sino que además pretende suplantar a los sindicatos tal y como otros grupos le han recordado por lo tanto

como la del grupo nacionalistas vascos como la del grupo socialistas son enmiendas que leídas nos parecen razonables pero que teniendo en cuenta que estos tres partidos políticos son los máximos responsables de los recortes sociales aplicados en euskadi y en el conjunto de españa en los últimos

por coherencia no votaremos a favor de ninguna de ellas

qué es de aquella transaccional que se aprobó en este parlamento en concreto el día siete de noviembre del año dos mil trece ustedes firmaron una transaccional en la que proponían y así se aprobó que este parlamento instara al gobierno vasco a que en el uso de su capacidad de autogobierno

todos los medios políticos y jurídicos a su alcance para no tener que aplicar las medidas impuestas

como es el caso de la congelación salarial anunciada para el año dos mil catorce

si era simple propaganda o se ha hecho algo gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jauna bertatik

muchas gracias señora presidenta desde el escaño con su permiso señora arrondo usted es una parlamentaria o una portavoz sindical o

es una función muy diferente igual usted no quiere o no puede distinguirla pero en cualquier caso nosotros sí y mire todos los sindicatos

en la mesa general si son propuestas razonables constructivas seguro que se llegarán a acuerdos si son irreales ilegales

no va a ser así intervencionista y dirigista su moción vuelvo a repetirlo y por concluir una cosa que remarcaba antes

no es la condición de empleador de los poderes públicos lo fundamental es que generen condiciones para crear empleo público o no
fundamentalmente no público muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

al señor maneiro hombre yo creo que esa pregunta será oportuna en la próxima semana en la comparecencia del director de relaciones con el parlamento y el cumplimiento de las proposiciones no de ley creo que él es el adecuado para responder de todas formas tuvimos ocasión durante el debate parlamentario también de hablar sobre estas cuestiones decirle a la señora arrondo que con el partido popular cuando ha iniciado mi intervención he dicho que estaba de acuerdo en el uso torticero porque él decía que no entendía muy bien la relación

y es en el uso torticero que han hecho ustedes del reglamento de la cámara legítimo por otra parte pero torticero también porque de lo que venía hablando en un principio su iniciativa por escrito que era del plan de empleo ha terminado usted hablando de empleo público que teniendo que ver en el nombre son aspectos que si usted se da cuenta en este parlamento se tratan de forma totalmente separada pero oiga ha conseguido usted traer al debate

están muy claras por parte de cada grupo y nosotros mantenemos nuestra enmienda que tiene matices que diferencian a nuestra enmienda de las demás nada más y muchas gracias

ekimena aurkeztu aurretik irakurtzea literalmente dice en primer lugar

de las leyes españolas claro entre ellas destaca la suspensión de la jubilación anticipada a

la renuncia incentivada de la condición de funcionario la supresión de complementos de la it la supresión de los trabajos del comité técnico de valoración que supone la imposibilidad de incrementar las retribuciones ez nabil asmatzen hau da

la revisión en clave restrictiva de la cobertura de puestos y sustitución de personal

de los costes de personal la formalización de propuestas de amortización de puestos de la plantilla etcétera

que afirma que en relación con la aplicación del real decreto veinte barra dos mil once también del gobierno de españa el de las medidas urgentes para corregir el déficit público dice que

horren ondorioz no se ha incrementado las retribuciones de la plantilla

y añade que la aplicación de estas medidas ha conllevado dolorosos sacrificios para la plantilla pero al tiempo ha traído una disminución sustancial del nivel de endeudamiento de la diputación foral de gipuzkoa en definitiva que la aplicación sostenía en el tiempo y conjunto de medidas ha dado resultados positivos

esaten duenean con pleno acatamiento a las previsiones legales del real decreto ley hogei barra bi mila hamabi baina okerrena da espediente horretan

gracias señora presidenta señorías buenos días más de un tercio de los alimentos que se producen en el mundo termina en la basura

sanos y comestibles se convierten en basura en desecho ochenta y nueve millónes de toneladas de alimentos se desperdician cada año en europa lo que significa ciento setenta y nueve

en españa son casi ocho millónes de toneladas de alimentos que se pierden cada año el ochenta y seis coma cuatro por ciento son sobrantes de las comidas españa es el sexto país que más comida desperdicia de europa

a la adopción de medidas urgente para reducir a la mitad en dos mil quince

y solicitaba a cada estado miembro la elaboración de un plan de acción contra el desperdicio de alimentos el gobierno de españa ya lo elaboró

el parlamento europeo relaciona estas pérdidas alimentarías con los malos hábitos de compra consumo y gestión de los alimentos que pueden evitarse el desperdicio se produce en todas las fases

en las que un alimento pasa hasta llegar al consumidor en la producción por la no recolección déficit de calidad por fenómenos

o por exceso de producción en la gestión y almacenamiento por problemas de transporte o temperatura en la transformación debido

en la distribución por el deterioro y manipulación por estrategias comerciales inadecuadas y la problemática ligada a las fechas de caducidad y consumo preferentes en los hogares por la gestión inadecuada de compra y consumo en la restauración por la dificultad de previsión de la demanda o debido a la gestión ineficiente de la compra de alimentos señorías desde el grupo popular entendemos

en beneficio de toda la sociedad es necesario desarrollar de forma coordinada actuaciones que contribuyan a facilitar un cambio de actitudes para lograr limitar el desperdicio alimentario los avances que se logren en la reducción del desperdicio de alimentos

de incrementar la producción agrícola en un setenta por ciento

a la creciente población mundial las pérdidas y el desperdicio de alimentos plantean cuestiones éticas económicas sociales nutricionales y ambientales y se debe buscar soluciones que en todo momento tengan en cuenta la seguridad

en el contexto de crisis económica en el que nos encontramos en el que la sociedad atraviesa un momento difícil y debido al cual se ha incrementado el número de personas

de vulnerabilidad social la reducción de este desperdicio alimentario sería un paso preliminar importante para combatir el hambre y mejorar el nivel de nutrición

desde el grupo popular estimamos necesario que el gobierno junto con los bancos de alimentos y asociaciones sociales integradas en la cadena de aprovechamiento de alimentos

si valoramos esta destrucción de alimentos desde el impacto ambiental la reducción de este desperdicio se puede apreciar un consumo mucho más sostenible de los recursos finitos como son el agua la tierra los recursos marinos utilizados para la producción por lo tanto

de los procesos que intervienen en la cadena alimentaria y conseguir una efectiva reducción de los alimentos que desechamos con este objetivo es necesario conocer fielmente cuáles son las pérdidas de alimentos que se producen en las distintas etapas

colaborar con los centros tecnológicos para avanzar en el conocimiento de la vida útil de los alimentos colaborar con los bancos de alimentos

con las entidades y organizaciones sociales mediante actuaciones acuerdos para el aprovechamiento de alimento señorías todos tenemos

alimentario nos afecta y compromete a todos

se han presentado enmiendas enmiendas que yo creo que contribuyen a

yo les agradezco las aportaciones porque sin duda muestran también su compromiso en este objetivo que debe ser un compromiso como les decía de todos hemos firmado una enmienda de transacción decir que en la enmienda de transacción instamos al gobierno vasco a que en coordinación con las diputaciones forales ayuntamientos y los diferentes agentes de la cadena alimentaria a desarrollar acciones

limitar las pérdidas y desperdicios de alimentos incrementar su aprovechamiento optimizar la cooperación social y reducir impactos ambientales entre las diferentes acciones a abordar queremos especificar

el impulso de cadenas cortas de distribución alimentarias más sostenibles impulso como les decía antes a la creación de una red solidaria para el aprovechamiento

sociales integradas en la cadena de aprovechamiento de alimentos decir que aquellos grupos que no han

también nos gustaría que apoyasen esta iniciativa nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

no puede usted con su enfado con el pp que no voy a decir si tiene razón o no o porque se le adelante en todas las mociones y proposiciones a sus intenciones no puede

es relevante y no puede simplemente decir ante un problema mucho más complejo de cómo lo ha simplificado usted decir que

el problema es del sistema neoliberal que es de unos señores que no sabe quién y de un modelo y

incluso a los consumidores todos somos responsables de esto todos empujados por un sistema o por nuestra propia conciencia pero todos yo en cualquier caso no venía a debatir hoy mucho porque yo estoy satisfecho de lo que creo que vamos a aprobar yo solo vengo

aunque algún número pueda ser reiterativo a dar números nada más de aquí al año dos mil cincuenta la producción de alimentos deberá incrementarse en el mundo en un setenta por ciento

se desperdician y en la ue como se ha dicho ochenta y nueve millónes de toneladas se pierde en toda la cadena

siendo los porcentajes en cada eslabón diferentes lógicamente en función del país o continente de el que hablemos en los países en desarrollo se pierde mucho más en producción cosecha y poscosecha

luego no es necesariamente el sistema alimentario el responsable de esto es otra cosa más compleja en europa se desperdician ciento setenta y nueve kilos

año el cuarenta y dos por ciento en los hogares el treinta y nueve por ciento en los procesos de fabricación el catorce por ciento en restauración y catering

es de doscientos veintidós millónes de toneladas que se acerca mucho a la producción alimentaria neta de áfrica subsahariana de doscientos treinta millónes de toneladas

al año hay que pensar que para producir un kilo de carne de vacuno soberana o colectiva

por ciento de alimentos que se quedan sin consumir suponen un uso inútil de enormes recursos hídricos como media los europeos tiran

como ejemplo en el reino unido si eliminasen todos los desperdicios alimentarios

equivaldría eliminar uno de cada cuatro coches que circulan por el país en euskadi desperdiciamos al año del orden de trescientos cincuenta millónes de kilos de alimentos en euskadi el desperdicio alimentario supera el valor de compra al año de seiscientos millónes de euros ya en el hogar

alimento por persona semana es decir sesenta millónes de kilos al año entre todas y todos los vascos en euskadi los consumidores estiman que el porcentaje de desperdicio alimentario es del cuatro por ciento cuando la realidad es que del dieciocho por ciento en los hogares

se desperdicia el dieciséis coma nueve por ciento de frutas y hortalizas

en definitiva es un problema de conciencia ético nutricional y medioambiental por todo ello se requiere de un trabajo

que desarrolle tareas como la de hacer estudios para mejor cuantificar esta realidad que hoy he contado promover y divulgar buenas prácticas efectuar campañas de concienciación

y promover cooperación entre todos los agentes de la cadena alimentaria sin olvidar la colaboración de los bancos de alimentos por mi parte y para terminar simplemente sugerir un par de ideas para que empecemos a concienciarnos y a mejorar

retiraría preventivamente y solo por dos meses la licencia de inventor

embasados porque en cuanto los abres o te lo comes inmediatamente o se seca el cincuenta por ciento yo

en envases en que la mitad se queda dentro y ahora que vamos a comer

se me ocurre una cosa de enorme importancia porque a veces huir al pasado

de reciclar alimentos por la vía de las croquetas

fuera de recuerdos hagamos lo que sea pero ha llegado el momento en que al menos en derredor a los alimentos

y volver a sentirnos emocionalmente solidarios y conscientes de la escasez la solución no es la soberanía

la solución empieza por la conciencia y por la conciencia del problema

que el exceso es un defecto muchas gracias eskerrik asko tellería jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

se combate eliminando las desigualdades y con un mayor reparto de la riqueza eso es evidente y para ello se necesitan políticas inclusivas y no

y que seguramente también todos tendremos que tomar conciencia lo cierto es que aparte de todo

los portavoces que me han antecedido en el uso de la palabra el grupo socialista va a hablar de una realidad que existe y que está surgiendo en este momento

que son las consecuencias más dramáticas de la crisis por desgracia que nos está afectando a muchas familias en el estado español y en menor medida también en la comunidad autónoma vasca

ya no solo afecta a los perfiles que tradicionalmente reflejaban las estadísticas se está detectando una nueva pobreza y también en la comunidad

me refiero a personas que trabajaban que se han quedado sin empleo que han terminado de cobrar la prestación por desempleo familias que viven del subsidio

de la renta de garantía de ingresos y de la prestación del complemento de vivienda y que ya ni siquiera cubren el nivel mínimo de subsistencia de las necesidades básicas hablo de la alimentación y de los gastos propios de la vivienda señorías estamos asistiendo a una nueva forma de pobreza no cierren los ojos

yo hablo de necesidad la de aquellas personas familias que pertenecían a la clase media al llamado estado de bienestar sí al estado de bienestar y que hoy sin embargo se encuentran en el umbral de la pobreza y a pesar en una edad de activación para el empleo no encuentran respuesta en el mercado laboral hay que dar números evidentemente pero números de personas en euskadi según la encuesta de pobreza y desigualdades sociales del dos mil doce publicada por el anterior gobierno vasco más de ciento cincuenta y siete mil personas viven en riesgo de pobreza es decir un siete coma tres por ciento del total de la población vasca no dispone de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas ese sí es un dato

y es la cifra más elevada en los últimos veinticinco años y esto yo creo que es una alerta informes recientes de organizaciones como cáritas

y dicen que afectan de manera muy particular al bienestar de los niños y de las niñas en euskadi la pobreza infantil ha pasado del tres coma cinco por ciento en el dos mil ocho al seis coma dos en el dos mil doce y afecta ya a treinta y cinco mil niños y niñas menores de quince años que viven en hogares

hasta el momento el sistema de garantía de ingresos parece haber tenido un impacto positivo en la contención de las tasas de pobreza de la comunidad autónoma del país vasco pero aún así

llega a fin de mes con dificultades o con mucha dificultad la crisis ha multiplicado el número de familias vascas

las necesidades de alimentos y de otros productos básicos ya no se concentran solo en personas sin techo o en situación de marginación social también en familias con un grado considerable de vulnerabilidad a las que las crisis está empujando a la pobreza

ha llevado a algunas organizaciones sociales sí señorías a algunas organizaciones sociales a denunciar el despilfarro de alimentos

debatimos hoy en esta cámara sobre cómo diseñar estrategias para aprovechar los excedentes alimentarios en la comunidad autónoma vasca y en este sentido

europeo del dos mil doce que determina las medidas y estrategias para evitar el desperdicio de alimentos y conseguir la mejora en la eficiencia de la cadena en toda la unión europea porque cada año se pierden en europa según las estimaciones hasta un cincuenta por ciento de alimentos sanos y comestibles se ha propuesto de hecho que este año dos mil catorce sea designado como año europeo contra el desperdicio alimentario

la gran mayoría de las cadenas de distribución de alimentos un setenta y ocho por ciento desecha comida que está a punto de caducar

o a organizaciones para su aprovechamiento los bancos de alimentos y las organizaciones sociales hacen una gran labor sí señorías hacen una gran labor eso no lo puede cuestionar nadie y desdehace muchísimos años pero en este momento no llegan a cubrir todas las necesidades que están surgiendo el grupo socialista

para que nos contasen la situación social que se vive actualmente en la comunidad

y ver cómo podemos lograr un mayor aprovechamiento de los excedentes alimentarios comparecieron en diciembre pasado y nos dijeron cómo atendían en la actualidad en torno a setenta mil personas y como están viendo que cada mes

dijeron que los bancos de alimentos pueden paliar puntualmente los efectos

demandaron más colaboración de las instituciones y una regulación que evite el despilfarro de productos defectuosos

y también una mayor coordinación con las diputaciones forales los servicios sociales de base de los ayuntamientos para garantizar el control del destino

realmente a las personas que necesitan estos alimentos y en este sentido formuló la enmienda el grupo socialistas vascos nosotros lo que pedimos en nuestra enmienda fue que el parlamento en principio el parlamento vasco instaba al gobierno de españa

que correspondan el mantenimiento de la financiación del programa europeo de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas para el periodo dos mil catorce dos mil veinte el parlamento vasco también insta el gobierno vasco y a las diputaciones forales

en el marco de las políticas de cohesión para la inclusión social los socialistas también instamos al gobierno vasco a crear una red solidaria y este punto es súper importante

los ayuntamientos la federación de bancos de alimentos de euskadi agentes económicos vinculados con la cadena alimentaria así como organizaciones y entidades sociales integrados en la cadena de aprovechamiento de alimentos a fin de promover acuerdos de colaboración y actuaciones tendentes para ese aprovechamiento y reparto de los mismos

se ha incorporado a la enmienda transaccional en la que también hemos firmado el grupo socialistas vascos y por último y atendiendo a las reivindicaciones

también el grupo socialista insta al gobierno vasco a regular legalmente

y la constitución de una cadena solidaria solidaria que no de caridad para el aprovechamiento de alimentos hemos firmado el acuerdo transaccional

es que los excedentes alimentarios no solamente se aprovechen sino que lleguen a las personas que realmente lo necesitan y esto se consigue

los servicios sociales de base de los ayuntamientos vascos también de quienes trabajan en la recogida de los alimentos y de quienes participan en el reparto me refiero a los bancos de alimentos y a las organizaciones sociales ellos ahora más que nunca están pidiendo nuestra colaboración señorías la colaboración de todos y de todas y también como no
de las instituciones vascas por mi parte nada mas muchas gracias eskerrik asko sarasua andrea

sí gracias presidenta creo que todos ustedes han aportado datos

muy interesantes yo diré alguna cosa que espero pueda servir para completar el argumentario y trataré de dar algunos datos

la mayor parte de los cuales ya se han planteado por parte de los distintos portavoces según un estudio publicado por la comisión europea la producción de residuos alimentarios en los veintisiete estados miembros de la unión europea

kilogramos por habitante que de continuar la tendencia actual podrían ascender hasta los ciento veintiséis millónes de toneladas en dos mil veinte

lo ha señalado parte de este desperdicio se debe a una mala gestión sobre las fechas de caducidad o consumo preferente de los alimentos así se estima que un veinte por ciento de los alimentos que se tiran se hacen por las dudas en relación

en españa este desperdicio de alimentos se cifra en siete coma siete millónes de toneladas siendo el sexto país que más desperdicia comida en europa según datos

asimismo según un informe del ministerio de agricultura alimentación y medioambiente en torno a un setenta y ocho por ciento de las cadenas de distribución de alimentos desechan la comida que está a punto de caducar mientras que solo el veinte por ciento se la entregan a un banco de alimentos

de los cuales dieciséis millónes reciben ayuda alimentaria de organismos de beneficencia esta situación justifica

iniciativas sociales que desde los poderes públicos se adopten medidas dirigidas a promover no solo hábitos de consumo razonables

que eviten su desperdicio en tal sentido la ley veintidós barra dos mil once de veintiocho de julio de residuos y suelos contaminados en su artículo quince establece que las administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales deben aprobar antes del doce de diciembre de dos mil trece

entre otras medidas se prevé específicamente que se aborde la generación de residuos de alimentos con medidas encaminadas a evitar el desperdicio de alimentos y fomentar

tales como acuerdos con los comercios para minimizar los alimentos caducados establecer pautas para consumidores restauradores y actividades con comedor

a través de iniciativas sociales como los comedores populares o los bancos de alimentos nosotros efectivamente no presentamos enmienda a esta iniciativa

esta iniciativa además se ha complementado de manera excelente por las aportaciones de otras enmiendas de distintos grupos nosotros sí que presentamos una iniciativa en relación a este asunto no hace demasiado en asturias y nosotros lo que propusimos allí y creo que también puede servir digamos para acompañar estas medidas que se plantean

al gobierno autonómico de asturias de elaborar un plan autonómico de aprovechamiento de alimentos con la participación de todos los agentes implicados con el objetivo de mejorar la eficiencia de los procesos para reducir los excedentes de alimentos aptos para el consumo pero para la comercialización de establecer mecanismos para que los excedentes de estos productos sean entregados a organizaciones sociales y distribuidos entre las personas con más necesidades a concienciar a toda la cadena alimentaria desde productores a consumidores de la necesidad de realizar un consumo responsable y de reducir el desperdicio

de asturias promover una gestión adecuada de los residuos generados por la actividad comercial con medidas dirigidas a su reducción y finalmente

la adopción de cuantas medidas fuesen necesarias para garantizar que todas las personas y familias sin recursos dispongan de la alimentación básica suficiente para su normal desarrollo en fin esto es lo que nosotros propusimos en asturias en este caso concreto no hemos planteado ninguna enmienda pero lo cierto es que vista la enmienda transaccional

no ha sido necesaria no era necesaria que nosotros

porque creo que en esta enmienda transaccional se recoge perfectamente bien todo lo que debería hacerse en relación con esta cuestión eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz

brevemente para en primer lugar agradecer al grupo

la enmienda de transacción para decir que creo que esta iniciativa va más enfocada a evitar excedentes

y los excedentes de desperdicio de alimentos más que a regular los excedentes alimentarios creemos que donde

debemos enfocar las actuaciones debe ser en evitar

como ya se ha explicado en las distintas fases de la cadena desde la siembra hasta que llega al plato y ahí son muchas las actuaciones que se pueden hacer

entendemos es normal que aquí se expliquen las

por enésima vez su filosofía en cuanto a la producción agraria

en cualquier caso creo que esta tarde tenemos otro punto mucho más concreto y donde como ya es habitual volverá a repetir el mismo
argumentario y entonces le contestaremos nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea lazarobaster jauna zurea da hitza

eskerrik asko muy breve yo agradecer el apoyo de bildu a la transacción sé que están de acuerdo y no puedo tampoco soslayar una crítica

puedan avanzar con la nueva estructura directiva que tengan pues

en el tema y simplemente volver a aclarar que aunque parezca que sí hoy en este tema no estamos hablando de ricos y pobres aunque siga habiendo ricos y pobres estamos hablando de que desperdiciamos todos alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria y

estamos hablando de que no valoramos lo que se pierde que más

unos por unas razones o por otras porque les hace mal tiempo y pierden un trozo de la cosecha pero en los países ricos que es lo que yo más conozco por opulencia porque no somos conscientes de lo que desperdiciamos y no podemos

sobre que el responsable es esto o sobre que la solución es lo otro no es así

y estará en el fondo del propio espíritu del ser humano

ya simplemente por terminar lo importante o intentando ejemplificar

pues tiene dificultades de entrar en el mercado tiene grandes dificultades porque la gente no está acostumbrado cuál es la clave qué es lo que pretendemos hoy

coma con tranquilidad esa zanahoria porque si

empiece a entender en su conciencia que está desperdiciando alimentos nada más muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

señor tellería usted no querrá hablar de ricos y pobres pero evidentemente es la realidad que hay en este momento con la crisis se acentúa esa brecha en la desigualdad evidentemente

y si desde luego algo está claro es que

necesidad y ya no queremos hablar de aquellos países donde existe el hambre porque hay una palabra que es el hambre en el mundo

los socialistas vascos lo que queremos dejar muy claro es que aquí hay que trabajar y que hay que trabajar

pero la realidad es la que es existen los bancos de alimentos existen las organizaciones sociales

con los servicios sociales de base y existen las personas que cada día de manera más masiva llegan a los servicios sociales de base a pedir alimentos porque eso es una realidad y si no

les invito a que pasen por los servicios sociales de base de sus ayuntamientos y se pasen una mañana allí y comprobarán que lo que esta parlamentaria dice es real

también se hace necesario ahora más que nunca crear esa red solidaria

sociales integradas en la cadena de aprovechamientos y que lo impulse el gobierno vasco la diputación en colaboración con eudel

de que surjan asociaciones que de alguna manera aprovechándose de la corriente no ejecuten esa labor de la manera más correcta

que puede pasar y que de alguna manera hay que tener en cuenta decirle al representante de upyd por aclararle que efectivamente el gobierno de asturias sí que va a hacer un plan de aprovechamiento de alimentos

upyd pero de cualquier manera cualquiera interpelación cualquier propuesta cualquier iniciativa en este sentido que

muchas gracias eskerrik asko sarasua anderea mistoak sí gracias

una iniciativa parlamentaria instando al gobierno de asturias para que pusiera en marcha

esa iniciativa no sé si a partir de ahí el gobierno de asturias

y se puso en marcha en todo caso señora sarasua esto no es importante gracias eskerrik asko maneiro jauna

sí muchas gracias presidenta esta es una iniciativa contra la impunidad de eta

a favor de las víctimas del terrorismo a favor de la sociedad decente y en contra de las mentiras de eta y de quienes les acompañan el pasado día veintiocho de diciembre el colectivo de presos de eta emitía un comunicado en el que reconocía el sufrimiento y daño multilateral generados como consecuencia del conflicto y donde se mostraba dispuesto a estudiar la posibilidad de que el proceso

que culmine con la vuelta a casa se efectúe de manera escalonada mediante compromisos individuales y en un tiempo prudencial el objetivo es sin renunciar a su historia y sin petición

salir cuanto antes de la cárcel este es el objetivo fundamental de los presos de eta y de algunos servicios auxiliares que les acompañan creo que a día de hoy podemos estar todos básicamente de acuerdo que ellos tienen ese objetivo

afirmaban los presos que podrían aceptar que su excarcelación se produjera utilizando cauces legales en ese comunicado los presos decían aceptar el nuevo escenario y manifestaban su renuncia expresa al método utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición

y vulneración de derechos asumimos decían toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias de las acciones y mostramos nuestra voluntad para analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes añadían

que somos rehenes de los estados español y francés y a través de sus funcionarios sufrimos el acoso del sistema carcelario construido para aniquilarnos

y reclamaban que los procedimientos judiciales sean revisados y evaluados y reparado el daño causado sobra decir que nosotros no queremos aniquilar a nadie sino que lo que queremos hacer es que se haga justicia en euskadi y en el conjunto de españa

y la política carcelaria añadía el comunicado que

pretenden ahogar entre los muros de la prisión el proceso democrático que la ciudadanía vaca trata de llevar

que no pretendemos ahogar a nadie en ningún lado pretendemos que se haga justicia que se aplique la legalidad vigente en definitiva el colectivo se mostraba dispuesto a tratar de que el proceso de solución a la cuestión de las personas presas sea escalonado basado en compromisos individuales y en tiempo es decir salir cuanto antes de la cárcel podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa otra vez volver a casa otra vez la excarcelación nuestra excarcelación

a euskal herria se efectuase utilizando cauces legales

para nosotros implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena es decir el objetivo de eta es la impunidad el objetivo de

sin reconocimiento del daño causado sin petición de perdón a las víctimas del terrorismo y a la sociedad y sin colaboración con la justicia

ojalá quisieran reinsertarse pero es falso que quieran reinsertarse solo quieren impunidad y salir cuanto antes de la cárcel

a ellos pero también al gobierno qué es lo que dice la ley para condicionar cualquier tipo de beneficio penitenciario al cumplimiento de lo que marca la ley nada más

su objetivo decía ser buscar un amplio consenso que posibilite nuestro regreso a casa otra vez su regreso a casa otra vez las excarcelaciones

nuestro carácter ni dignidad política leído el comunicado es obvio que no hay en él un atisbo de arrepentimiento ni gesto alguno de solicitud de perdón a las víctimas si no hay arrepentimiento y si no hay petición de perdón

no puede haber reinserción y no puede haber tampoco beneficios penitenciarios sin arrepentimiento y sin petición de perdón

reinserción el comunicado está plagado de las mentiras habituales desplegadas históricamente por el mundo de eta realiza un ejercicio de victimismo insoportable para la sociedad democrática y presenta a los presos etarras condenados por delitos tipificados en el código penal como presos políticos

español y francés todo esto se dice en ese comunicado es obvio que el colectivo de presos con aquel comunicado y en general

representaciones y actos están presionando y están exigiendo al gobierno de españa tanto más ventajas políticas

resquicios legales para alcanzar la excarcelación de los presos está bien que acepten la legalidad nosotros pedimos que se aplique toda ella y se lo pedimos al gobierno de españa es ante esta pretensión de lograr impunidad para los terroristas

esta iniciativa parlamentaria para instar al gobierno de españa a que en el desarrollo y la aplicación de la política penitenciaria que aplique a los presos condenados por terrorismo y para evitar cualquier tipo de impunidad o injusticia aplique y estrictamente el código penal la ley general penitenciaria y el reglamento penitenciario cosa que en nuestra opinión no lo ha hecho el gobierno de españa

al cumplimiento por parte del preso de todos los requisitos legalmente establecidos sin excepción que por otro lado son requisitos perfectamente democráticos

desvinculación definitiva de la banda terrorista petición de perdón a sus víctimas por cierto el perdón tiene que ser público el daño cometido

contra la convivencia por lo tanto el perdón tiene que ser público asunción de la responsabilidad civil derivada de las acciones por las que fue condenado y

y acreditada con las autoridades y la justicia que permita además resolver los crímenes cometidos por eta pendientes de resolución a día de hoy más de trescientos ya digo requisitos absolutamente razonables y entendibles si los presos de eta no quieren cumplir estos requisitos

que no aplique ningún tipo de beneficio penitenciario pero ha ocurrido se han concedido beneficios penitenciarios

que no habían cumplido estos requisitos lo cierto es que una iniciativa semejante fue debatida en esta cámara a propuesta de upyd

y no fue apoyada por ningún grupo ante la pretensión de eta y del mundo de eta de tratar de lograr impunidad para sus presos defendemos esta iniciativa para defender

y la justicia que implica el cumplimiento estricto de la legalidad vigente sin trampas de ningún tipo rigurosa y estrictamente cosa que por cierto

si de verdad se quiere hacer justicia impedir que haya ningún tipo de impunidad y lograr que sean aclarados todos los crímenes cometidos por eta todos los grupos deberían votar a favor

del veintiocho de diciembre y su anuncio posterior de solicitar excarcelaciones y beneficios

vistas las noticias de los últimos días en relación a esta cuestión es a nosotros nos parece absolutamente imprescindible recordar la legalidad vigente y recordar al gobierno de españa que debe aplicar esa legalidad vigente la legislación actual obliga a los presos de eta a romper con la banda

para que puedan acceder a beneficios o para que puedan ser excarcelados unos requisitos que van más allá de la asunción genérica del sufrimiento y el daño multilateral generado

que la otorgan los jueces y permite no volver a prisión

estar clasificado en tercer grado penitenciario haber cumplido

favorable de reinserción social según establece el código penal se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado inequívocos de haber abandonado los fines de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades para la identificación captura

la ley por lo tanto está clara porque efectivamente la muestra definitiva de que un preso está arrepentido de que su petición de perdón si se produce no es falsa y de que está reinsertado o puede reinsertarse en la sociedad es su colaboración con la justicia

no se arrepiente no se ha arrepentido de sus actos si se niegan a colaborar con la justicia es que no están reinsertados ni quieren reinsertarse y además no se cumple uno de los requisitos para acceder a los beneficios penitenciarios establecidos en la ley

con la única condición de volver al centro para dormir la decisión de los grados de cumplimiento recae instituciones penitenciarias el artículo setenta y dos punto seis de la ley general penitenciaria señala que la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales requerirá

por el código penal y la satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros en los términos del apartado anterior que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas y otra vez que hayan colaborado activamente con las autoridades creo por lo tanto

es cuestión de garantizar que no haya ningún tipo de impunidad esto es lo que nosotros les pedimos a ustedes y pedimos al gobierno de españa con esta iniciativa

que no permitamos que el gobierno de españa otorgue beneficios penitenciarios como ha ocurrido en el pasado a presos de eta que no se han arrepentido que no han pedido perdón que no han colaborado con la justicia creo que en fin ya digo la iniciativa es meridianamente clara es de justicia

que es una iniciativa en contra de la impunidad a favor de la justicia a favor de la sociedad decente a favor de las víctimas

frente a ese llamamiento en términos positivos en términos de responsabilidad

viene a incidir en las mismas actitudes irresponsables de siempre en la misma línea de mantener la política penitenciaria como un problema enquistado obstáculo en vez de parte de una solución vienen a apuntar siempre una nueva dificultad a remover de nuevo ese listón siempre en alza invocando esta vez la aplicación rigurosa del código penal

reformado para ser más severo más cruel más inhumano un código penal

por la emergencia antiterrorista un listado de disposiciones ad hoc para este colectivo siendo que la legislación ordinaria no determina semejantes requisitos un tratamiento excepcional que a su vez indica la excepcionalidad del colectivo

se introdujeron por medio de una reforma del código penal en el año dos mil tres denominada medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas

en su totalidad un catálogo de requisitos generales impuestos de manera conjunta si bien muchos de ellos no son operativos si atendemos al caso es entonces cuando el colectivo de presos políticos vascos

y nos hacen cambiar de paso a todos es cuando asumen el nuevo escenario renunciando a los medios del pasado tal y como bien ha mencionado el proponente

los hechos que les llevaron a prisión es cuando los presos demandan la verificación individual de las circunstancias de cada uno de ellos y ellas caso a caso asunción que debe tener además efectos normativos sin embargo parece que ustedes prefieren quedarse en la trinchera aquellos requisitos inmutables diseñados ex profeso para los presos de este colectivo unos requisitos que no cuadran con el artículo tres de la ley general penitenciaria la actividad penitenciaria se ejercerá dice respetando en todo caso la personalidad humana de los recluidos sin establecer diferencia alguna por razón de raza opiniones políticas

otra circunstancia de análoga naturaleza unos requisitos que invocan pero que chocan a su vez con la legislación ordinaria ya que el artículo cien punto dos del reglamento penitenciario tiene por título clasificación penitenciaria y principio de flexibilidad

que respecto a cada penado se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno

principio de flexibilidad léanlo también legal un apunte esta legislación entró en vigor en dos mil tres pero nuevamente con vocación de aplicarla de forma retroactiva a situaciones anteriores a ese año al dos mil tres

con esto pretendieron cerrar el paso a la legislación ordinaria que se aplicaba a aquellos presos políticos condenados con el código penal de mil novecientos noventa y cinco nuevamente se reincide se cae por esa pendiente resbaladiza por el error de lo que fue la denominada doctrina parot nuevamente

con carácter retroactivo ya conocemos el resultado que ante el tribunal europeo de derechos humanos tuvo aquella doctrina ustedes inciden en ciertos requisitos legales que ahora se deberán de verificar desde el prisma de los compromisos que asumen los miembros del eppk habrá que dejar hacer a las juntas de tratamiento al juez central de vigilancia penitenciaria e incluso a otros órganos superiores hasta tal vez el propio tribunal europeo

ver como interpretan esas nuevas circunstancias y si casan o no en esos requisitos que ustedes invocan requisitos que me temo no los imponen para que sean cumplidos sino precisamente para que no se puedan cumplir gaur aipatu behar dut baita ere larria izan delako

bien señor maneiro trae usted aquí una iniciativa referida a la política penitenciaria política que tiene en la ley general penitenciaria y en su reglamento las bases para la clasificación de los penados en grado y la aplicación de los beneficios penitenciarios

quiso utilizar un criterio que fue ratificado después por la reforma penal del dos mil tres consistente en que la concesión de los beneficios penitenciarios solo pudiera hacerse a presos terroristas mediante el cumplimiento de determinados requisitos

que los casos de los delitos de terrorismo por la aplicación del artículo setenta y seis del código penal que establece que el cumplimiento máximo es de cuarenta años el cumplimiento debiera ser

haber observado buena conducta y contar con un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social emitido por la autoridad penitenciaria

solo puede ser positivo para los condenados por delito de terrorismo en aplicación de lo dispuesto en el artículo noventa del código penal cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades para bien para impedir la producción de otros delitos bien para atenuar los efectos de su delito bien para la identificación captura y procesamiento de los responsables

pruebas o impedir la actuación o desarrollo de las organizaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón

anunciaba por primera vez su disposición a asumir las medidas individuales contempladas en la ley para acogerse a los beneficios penitenciarios parecía solo parecía

de que dejaba así la línea mantenida siempre en la que los presos eran un apéndice más de la manda

parecía que se abandonaba la postura mantenida durante décadas por los presos de eta negándose a asumir los requisitos que exige la legislación penitenciaria en esta materia

a los presos de eta para que de manera individual pudieran decidir si se acogían o no a la reinserción

ha expulsado cuando no asesinado como dije el otro día en comisión y si no que se lo pregunten a la familia de yoyes a todos aquellos presos que habían decidido acogerse a las políticas de reinserción

solo era más de lo mismo seguía utilizándose lenguaje lleno de falacias insoportables

secuestrados por los estados enemigos el español y el francés y ninguna referencia al arrepentimiento

dejaban claro que la aceptación de los beneficios penitenciarios era una aceptación

únicamente para conseguir la vuelta a casa y utilizaban frases como que están dispuestos a asumir las responsabilidades sobre las consecuencias de su actividad política en el conflicto frases como estas que están en las

o de la violencia porque no hubo una actividad política lo que hubo es una actividad criminal

en el que lo que se hacía es exigir al gobierno que cambiase su política penitenciaria

en este comunicado señalaban que se les había malinterpretado en el comunicado anterior en el que anunciaban que asumirían la legalidad es decir se corregían a ellos mismos

desde ese primer comunicado y ningún preso de eta había realizado su petición individual que viniese acompañada de los requisitos que exige la ley para acogerse a los beneficios penitenciarios el comunicado de diciembre lo que vendría a señalar es que no aceptaban la

se modificase y esas exigencias viene siendo realizados por quienes también en una actitud poco responsable parecen querer compartir el papel de portavoces del colectivo de presos etarras

debieran estar dirigidas a eta y a sus presos es eta la que tiene que desaparecer

una apuesta sincera por la resocialización pasa porque se exija a los presos de eta que se desmarquen de la organización que renuncien a la violencia que pidan perdón a sus víctimas

de esclarecer pasa por la desaparición de eta

y a sus presos de que cumplan los requisitos legalmente establecidos

en el comunicado de finales de enero lo que solicitaban era que se modificase la legislación y se alejaban de soluciones individuales porque lo que querían era una solución integral pero la solución es clara y es la de siempre

y que ya he mencionado antes lo demás sería la concesión de privilegios la solución es el cumplimiento de la ley no las interpretaciones interesadas de esa ley como las que quieren hacer algunos es el cumplimiento de la ley y no los privilegios lo demás es propaganda que ya se preveía que se iba a realizar mediante la campaña mediática que se está realizando propaganda a la que tanto nos tienen acostumbrados el mundo de eta y esa querencia de algunos

de eta y de sus presos portavoces

de cambios de la política penitenciaria política que siempre ha tenido la finalidad de dividir a los reclusos de eta para facilitar su reinserción

política además que recibió para bienes de destacados dirigentes nacionalistas

la modificación vendrá de la desaparición definitiva de eta de su disolución de la entrega de las armas del reconocimiento del daño causado de la colaboración con la justicia para la esclarecimiento de los hechos pendientes

no sigan dirigiendo sus exigencias al estado de derecho el balón no está en el tejado del estado de derecho ni en el tejado del gobierno el balón está en el tejado de eta y en el tejado de los presos de eta

los que tienen que decidir acogerse a la ley a los requisitos que están establecidos en la ley sin pedir privilegios sin pedir medidas de gracia sino simplemente el cumplimiento de la ley y la enmienda que nosotros hemos presentado que es muy parecida a su iniciativa señor maneiro por qué lo hemos hecho porque tiene

que no le tiene que exigir al gobierno que cumpla porque el gobierno ya lo viene haciendo y dos que no le tiene que decir al gobierno qué leyes tiene que cumplir el gobierno sabe perfectamente qué normas tiene que cumplir las que nos hemos dado entre todos

qué es lo que establece la legislación y lo que va a hacer es lo que ha hecho

siempre cumplir la ley y aplicar el estado de derecho porque lo he dicho aquí en otras ocasiones y lo quiero reiterar hoy

a su derrota no es una convección ética o moral

no nos engañemos es la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado la actuación de los jueces la aplicación de la ley la movilización de la sociedad y la exigencia

no vendrá de rebajar esas exigencias sino del trabajo conjunto de todas las instituciones

y de todos los partidos democráticos así conseguiremos

gracias señora presidenta señorías quiero en primer lugar expresar la preocupación de los socialistas vascos por lo que viene siendo una reiteración de

las consecuencias de tantos años de terrorismo en este parlamento debates que después se ponen de manifiesto que solo sirven para generar división enfrentamiento confrontación o al menos que cada uno se coloque en sus trincheras

ese es un camino equivocado también queremos expresar nuestra preocupación por lo que viene siendo la proliferación de declaraciones de responsables políticos

institucionales que puedan dar algún momento de protagonismo pero que no contribuyen a generar la suficiente confianza para juntos acordar la política que tenemos que hacer para acabar definitivamente con eta

por eso los socialistas que ahora estamos en la oposición estamos dispuestos a arrimar el hombro como siempre con los gobiernos

al gobierno vasco y al gobierno de españa responsabilidad discreción altura de miras

para abordar la política penitenciaria nosotros no vamos a contribuir

a regalarle el protagonismo del cierre de eta a eta o a quienes están durante tanto tiempo le dieron apoyo y cobertura no lo vamos a hacer vamos a seguir manteniendo

y la firmeza pero también el trabajo de búsqueda de consensos y de acuerdos que hemos practicado siempre nuestra política penitenciaria es conocida la que defendimos y practicábamos cuando estábamos en el gobierno aquella que permitió que aquellos presos que cumplían los requisitos de nuestra legislación penitenciaria

la llamada vía nanclares aceptamos si quieren

el camino que los presos tienen que recorrer para si quieren reinsertarse en la sociedad cumpliendo todos los requisitos que la ley establece

por eso no vamos a respaldar su iniciativa señor maneiro porque

que tiene que cumplir la legislación vigente las leyes y la legislación penitenciaria y nosotros hemos dicho con mucha claridad cómo queremos que se cumpla con estricto cumplimiento de la ley pero que esa política

permita la reinserción de los penados

no le tenemos que recordar al gobierno que cumpla las leyes el gobierno sabe muy bien que tiene que cumplirlas y antes de finalizar algunas aclaraciones referida a la enmienda

ustedes hablan en su enmienda de presos políticos y los presos de eta no son presos políticos son presos terroristas

por cometer asesinatos sí asesinatos muchos asesinatos o por colaborar con una banda terrorista para que pudiera cometer todas las acciones terroristas que luego cometió

y otra aclaración más la legislación penitenciaria no es una legislación de excepción es la legislación que permitió precisamente que

es por cierto la legislación que van a tener que seguir los presos de eta

recorrer el camino de la reinserción ahora que ustedes van por detrás de los presos creo que lo que sería útil es que les animaran

que son muy sencillos algunos de ellos muy claros reconocer el daño causado alejarse de la violencia

creo que ustedes tienen un papel muy importante en este camino y con discursos

o con discursos de legislación de excepción poco contribuyen a ello gracias eskerrik asko ares jauna

denok bete behar dugu legea eso es lo único que podemos estar de acuerdo

y punto ahí acaba cumplimiento de la ley sin adjetivos sin adverbios ni máximo rigor ni manera estricta ni de forma laxa

tuvieron algún sentido que en nuestra opinión no lo tuvieron pero si las medidas

sentido antes cuando eta estaba en plena acción terrorista

ningún sentido a partir del final de la actividad armada de eta por lo tanto la desaparición

no tiene que estar al albur del interés político de cada momento los presos todos los presos los de eta también tienen derecho a la reinserción y a la resocialización por lo tanto

no debe estar condicionado a que los presos adopten una u otra postura porque es una medida excepcional que no tiene justificación

existe actividad terrorista otra cosa es la postura los requisitos para acceder a los beneficios penitenciarios y para eso yo creo que es fundamental uno

por parte de los presos de hacerlo y eso qué supone desvincularse de eta lo fantástico sería

pero mientras eso se produce la desvinculación efectiva de eta por parte

sencillamente eso sin medias tintas sinceramente y acogiéndose a medidas individuales que es lo que además ellos mismos han dicho

sin que sea como cuando se ha hecho en otras ocasiones el reconocimiento del daño causado

otros a los que por cierto se insultó se les acusó se les marginó

no hay presos políticos los presos que están en las cárceles están en las cárceles por haber cometido delitos perfectamente tipificados en el código no hay presos políticos usted habla de lo de siempre de mismas actitudes irresponsables de obstáculos de una nueva dificultad

del listón que se eleva para exigir el cumplimiento de la ley a los presos de eta habla de crueldad de inhumanidad

qué hay de extraño qué hay de antidemocrático en plantear y esta en la ley exigir a los presos de eta petición de perdón

colaboración con la justicia romper con la banda como condicionantes para acceder a ningún tipo de beneficio penitenciario dónde está la inhumanidad

varios portavoces que han planteado estos requisitos no solamente como perfectamente legales sino también como requisitos que deben cumplirse y es lo que nosotros queremos

que les parece bien que los presos de eta hablen y en cuanto hablan organizan charlas y ruedas de prensa pero al parecer pretende que este parlamento

y se posicione si ustedes señor iturrate señor ares están de acuerdo en que debe cumplirse la legalidad de manera clara rigurosa si se quiere que se cumpla la ley

busca una exigencia al gobierno de españa ante la pretensión de los presos de eta de excarcelarse de salir a la calle y de no cumplir la legalidad y por lo tanto es un asunto fundamental en euskadi a día de hoy cómo no se va a posicionar en relación a esta cuestión este parlamento

la sociedad nunca ha estado en ninguna trinchera ustedes han estado en una trinchera en la trinchera

a la sociedad pacífica ustedes sí ustedes sí señora llanos el gobierno de españa

no exige el cumplimiento riguroso de los requisitos establecidos antes de conceder beneficios penitenciarios y usted lo sabe perfectamente bien no ha habido presos que han accedido a beneficios penitenciarios de manera fraudulenta para reducir penas

sin haber colaborado fehacientemente y claramente con la justicia

decenas y decenas durante los últimos años esta es la realidad

y todas las víctimas este es un hecho que está ahí perfectamente demostrado no se ha exigido colaboración con la justicia en concreto para además de hacer justicia tratar de resolver los crímenes cometidos por eta el gobierno de españa tiene que ser más riguroso en el cumplimiento de la ley por lo tanto una iniciativa que plantea defender la justicia y creo que hay que terminar con algunas falacias

y no pueda y es falso también que los presos de eta quieran reinsertarse

esto es absolutamente falso si quieren reinsertarse que cumplan los requisitos establecidos en la ley para recibir beneficios penitenciarios pero cómo va a estar

que se niega a reconocer el daño causado imposible es decir no quieren no quieren esta es la conclusión una iniciativa por lo tanto de la justicia y en contra de la impunidad que creo que todos los grupos de esta cámara los grupos democráticos podrían perfectamente votar porque además en sus discursos han venido a plantear que efectivamente es esto lo que esta escrito en la ley y que los presos de eta deben cumplir la ley por lo tanto podrían votar

omen zarete precisamente upyd y pp nuevamente además de ser los impulsores de estos requisitos los más severos posibles los que supongan una política penitenciaria lo más

además actúan como sus únicos intérpretes se instauran en cierta manera en juntas

en jueces centrales de vigilancia penitenciaria en órganos supremos superiores y quién sabe si no también tal vez en jueces del tribunal europeo

que han ganado la batalla pues bien no sé quiénes son los vencedores tal vez son los últimos que se quedan en el campo de batalla ejerciendo violencia ejerciendo una política penitenciaria extremadamente violenta porque en ese ámbito les tengo que reconocer que sí que son ustedes verdaderos campeones

los presos vascos se consideran secuestrados rehenes del estado y cuando se dice que para aflojar la política penitenciaria eta se debe disolver

puede considerar por otros medios que la quiere conseguir poniendo más presión sobre los presos reduciendo sus condiciones de vida dificultando

si se persiguen esos fines odiosos esos fines bastardos entonces sí tenemos que considerar que son rehenes

tiene que ser por medio de la legislación sin embargo existe una legislación especial

ordinaria de cuál nos habla cuál es la legalidad a la que se tienen que someter cuál es la legalidad que deben

una legislación de excepción que además trata a un colectivo concreto de una manera absolutamente especial y excepcional precisamente lo cual les dota también no solo pero también de un carácter político creo que todos visualizamos que este colectivo tiene una vertiente política por el contexto en el que surgen por el tratamiento que reciben y por el debate que suscita

gracias señora presidenta señor arzuaga usted le preguntaba

y preguntaba que quién ha ganado la batalla la democracia yo comprendo que usted esos términos le suenan extraños

muy extraños porque ustedes todavía siguen sin condenar la dictadura de eta entonces hablar de democracia de sociedad democrática

muy extraño y avanzar a usted que tanto le gusta hablar de avanzar y no mirar al pasado avanzar supondría eso que usted de una vez

a la democracia a la sociedad democrática y pida a eta que se disuelva incondicionalmente que reconozca el daño causado y que pida perdón a las víctimas por todo el dolor causado yo hablaba de obscenidad

en el comunicado que dan el veintiocho de diciembre pero es que usted es igual habla de severidad de crueldad de inhumanidad

de verdad y es incapaz de reconocer la severidad la crueldad y la inhumanidad

durante tanto tiempo y habla de actitud irresponsable de quién

de quién es la irresponsabilidad suya suya

por no acogerse a lo que es la democracia y habla de que la ley general penitenciaria en su artículo tres no permite

por opiniones políticas que no son opiniones políticas que el tratamiento a los presos de eta es porque tienen un tratamiento específico a los terroristas como banda organizada que la dispersión no es una medida de excepción solo para la banda terrorista eta es para las bandas organizadas y le diré que en europa se utiliza esa medida es una medida

es una medida que se utiliza a las bandas organizadas precisamente para evitar que el control de las bandas ejercen sobre sus propios presos que no es una legislación de excepción

cómo podrían dejar de cumpliendo la ley lo beneficios penitenciarios cumpliendo la ley y dejando de ser una banda terrorista dejando de pertenecer a una banda terrorista

en ese caso dejarían de ser presos terroristas y no se le aplicaría la legislación penitenciaria establecida para los terroristas porque sí pero porque existe

porque son una banda organizada y en el resto de europa esa legislación también existe

de que en el pasado la política de dispersión no tenía sentido yo les voy a leer unas frases todo lo que sucede en torno a los presos de eta no es algo que se haya inventado aquí

es en primer lugar un factor movilizador eta necesita mantener a los presos unidos y con moral de combate

a través de la negociación el que un colectivo en concreto

en una o varias cárceles no parece que pueda considerarse exactamente un derecho

luego eso de que nunca ha tenido sentido este tipo

en otros momentos y usted yo comparto algunas cosas de las que ha dicho señor maneiro lo que no comparto es lo que dice usted del gobierno no lo comparto

esos supuestos fraudes que usted dice porque mire le tengo que decir que es que claro al gobierno del partido popular se le critica

por la contraria y le voy a leer también una primera consideración

en política penitenciaria es que lo que ha hecho es retroceder es que no concede ningún permiso es que ni tan siquiera pone

el señor jesús loza el señor jesús loza que antes estaba aquí acompañándonos luego le digo señor maneiro criticarnos por una cosa y por la contraria

de mariano rajoy está muy bien porque vamos es algo a lo que se apunta todo el mundo pero en fin cuando uno critica por lo menos que critique con

y yo para finalizar solo quiero compartir una reflexión que ha hecho el señor ares efectivamente el protagonismo

ni otros que quieren escribirlo igual que eta ha acabado porque la democracia la ha vencido y lo quiero volver a decir aquí porque la democracia la ha vencido quien tiene que escribir el final de eta es la democracia

tienen que cumplir la ley y todo pasa por el cumplimiento de la ley y como he dicho antes que rompan ese cordón umbilical los presos de eta que han tenido con la banda terrorista eta durante mucho tiempo

y si se quieren acoger a los beneficios penitenciarios ya saben lo que tienen que hacer cumplir con la ley nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea ares jauna zurea da hitza

su grupo se empeñen en hablar de presos políticos o por motivaciones políticas

legislación de excepción por mucho que se empeñen en hacer el discurso tradicional de batasuna que tiene como objetivo muy claro diluir responsabilidades

de apoyo y justificación al terrorismo que tiene como objetivo blanquear en la medida en que se pueda la historia macabra de eta

porque en frente nos tendrán a los socialistas nos tendrán a los socialistas para

la verdad de lo ocurrido para que prevalezca la justicia y para construir el futuro sobre bases

nosotros estamos dispuestos a mirar al futuro se lo he dicho en otras ocasiones pero no estamos dispuestos a colaborar con ustedes para que ustedes no asuman sus responsabilidades y que eta asuma las suyas ese es lo que ustedes tienen pendiente

porque si no les puede pasar lo que le he dicho antes que incluso hasta los presos de eta vayan por delante de ustedes

probablemente le queda mucho por hacer todavía a los presos porque no valen con declaraciones colectivas tienen que ser decisiones individuales declaraciones individuales personales intransferibles para recorrer el camino de la reinserción pero

ustedes todavía de vez en cuando hablan de modificación de la legislación de vaciar las cárceles

probablemente sea un discurso para su parroquia poco efectivo y poco

nosotros defendemos con claridad que los presos que cumplan todos los requisitos puedan recorrer el camino de la reinserción y eso se llamaba vía nanclares y no sé qué problemas tiene usted señor maneiro con ella

ningún problema si eso facilita las cosas pero lo más importante para poder avanzar es que todos animemos a los presos especialmente ustedes

menos escenificación menos impostura menos trucos señora llanos como el de

de la chistera el conejo las palabras de arzalluz que por otra parte aquí han sido objeto de debate en muchas ocasiones el propio señor

de dispersión de presos qué es lo que pretendía a dónde llegó que no consiguió los objetivos previstos y la postura del partido nacionalista respecto

es muy clara y muy rotunda desde hace muchos años por lo tanto deje los conejos en la chistera que están bien allí y no enredemos el ambiente más de lo necesario

dos mensajes que creo que son muy claros a dos extremos que se han manifestado en esta sesión de hoy

al señor arzuaga que seguía la estela que ha abierto hoy

acusando denunciando la falta de sensibilidad del lehendakari en relación con los presos de eta y que usted ha insistido

un mensaje muy sencillo y muy claro los presos

y a la resocialización que han tenido todos ustedes que ha tenido

un minuto un minuto se tardó en presentar los estatutos de sortu en el registro de partidos políticos un minuto en recibir el sello

en reinsertarse en la vía que se pretende para los presos de eta un minuto en acatar la legalidad vigente con todas las consecuencias acatar la constitución solo les faltó

por lo tanto ese minuto no se por qué lo tienen que convertir ustedes en un vía crucis para los presos de eta pueden hacerlo igual que lo hicieron ustedes igual que ustedes acataron la legalidad española

sin ninguna salvedad y para lo que tardaron un minuto por lo tanto no alarguen ustedes más y no nieguen a los presos de eta aquello que han favorecido y el camino que han seguido ustedes solo les pido eso y a los demás

de gobierno que tiene menos pose menos demostraciones de quién es más duro porque esto señora llanos esto es un parlamento esto no es el casting para ver quién es

quién es el más duro y quién saca más pecho en defensa intereses aquí lo que hace falta es más trabajo más discreción y más acuerdos y para eso señora llanos
y señor ares también ya saben donde estamos está la ponencia paz y convivencia que les está esperando nada más eskerrik asko iturrate jauna